muchas gracias presidenta gracias

efectivamente este no es un pleno de política general ni es un pleno sobre los presupuestos vascos pero comprenderá usted señor lehendakari

de lo que será capaz de hacer de ahí que al menos en nuestro caso hayamos querido recordarle qué es lo que ustedes han hecho o más bien qué es lo que ustedes no han hecho

que ha presidido su actuación política en estos primeros cinco meses es obvio que es fundamental recordarle también la situación de soledad en la que se encuentra por lo tanto es obvio que no es un pleno de política general no es pleno de presupuestos pero había que poner encima de la mesa todas estas cuestiones porque

y vemos lo que ustedes han hecho difícilmente podremos ser optimistas sobre lo que ustedes plantearán en el futuro en todo caso ustedes han presentado aquí

que no tiene apoyos ustedes han presentado un programa de gobierno que el resto de la oposición rechaza por lo tanto la pregunta a realizar

con quién va a llevar a cabo este programa de gobierno y en qué queda una vez que escuchemos su propuesta de pacto de estabilidad que supongo usted trasladará a algunos y solo algunos partidos de esta cámara en todo caso yo señor lehendakari le quiero decir también algunas cosas

le quiero decir que upyd ha actuado durante cinco meses de manera constructiva efectivamente tenemos un solo parlamentario como a veces se nos recuerda

hemos mostrado una actitud constructiva sabemos que tenemos un solo parlamentario sabemos que posiblemente sea el parlamentario que más les incomoda a ustedes pero en todo caso nosotros hemos ejercido nuestra responsabilidad y en todos los asuntos y en todas las materias

al diálogo y usted lo sabe bien upyd no ha formado parte de ningún bloque de boicot o bloqueo y creo que usted

la señora quiroga hemos defendido nuestras propuestas

tanto en este parlamento como en el trámite presupuestario y creo que usted lo sabe bien hemos planteado una serie de propuestas un documento con dieciséis propuestas muy concretas a la hora de debatir para sacar adelante el proyecto de presupuestos lo que ustedes pretendían es que nosotros dijéramos amén

les entregáramos un cheque en blanco y nosotros obviamente como ustedes comprenderán no vamos a hacer eso en ningún pero es que incluso ni siquiera cuando el pp estaba dispuesto como se veía a aprobar los presupuestos sin nada a cambio sin plantear ninguna propuesta alternativa incluso en esa situación

y a negociar con upyd nosotros presentamos una serie de propuestas para el diálogo y para el acuerdo ustedes nos dijeron en relación a su proyecto de presupuestos esto

lo mejor de nosotros mismos y en todo caso es lo que va a seguir haciendo upyd

y la mejor forma de actuar que tiene es seguir planteando las propuestas que hemos venido defendiendo hasta ahora

otro es obvio que euskadi necesita un gobierno fuerte y activo que active las medidas que los ciudadanos necesitan

es obvio que no lo tenemos no tenemos ni un gobierno fuerte ni un gobierno activo ni parece que reflexione

ni planifica ni actúa tenemos justo por lo tanto lo contrario un gobierno débil un gobierno sin apoyos un lehendakari en minoría y sin liderazgo

en la más absoluta soledad hemos escuchado al partido popular nuevamente ofrecerse

pero lógicamente ni así llegarían a la mayoría parlamentaria

o escuchado a usted mismo en fin no parece y es lo más triste que haya ningún tipo de propósito de enmienda

y al gobierno es paciencia yo creo que no es cuestión de paciencia es cuestión de que ustedes se den cuenta que están en minoría y por lo tanto necesitan

que hacer no ejercitar la paciencia no estar plantados

sino moverse y comprender que ustedes están en minoría por lo tanto

no se dan cuenta de esta situación lo cierto es que usted ha venido a plantear y parece que lo va a hacer en la próxima intervención un pacto de estabilidad

voluntariamente es el único partido político al que ustedes dado que al parecer eh bildu se autoexcluye pero ustedes al único partido político que excluye de ese pacto de estabilidad es a upyd en fin hagan ustedes lo que consideren en relación a ese pacto de estabilidad nosotros tenemos claro qué es lo que euskadi a día de hoy necesita lo que a día de hoy necesita euskadi se lo he planteado también en mi primer turno

que euskadi necesita y que también estaban planteadas en ese documento con esas dieciséis propuestas reforma fiscal que sirva para garantizar el estado del bienestar

reforma profunda del entramado institucional incluyendo la modificación de la ley de territorios históricos racionalización y redimensionamiento del sector público y medidas para luchar contra la crisis crear empleo incentivar la actividad económica apoyar el tejido productivo y relanzar

parece que no quieren hacer todo lo que ustedes no han hecho en estos cinco meses de gobierno en la más absoluta soledad en definitiva lehendakari ustedes están paralizados nosotros no nosotros vamos a seguir trabajando

para rescatar a los ciudadanos de la crisis para modernizar euskadi y poder salir cuanto antes de la situación en la que nosotros y todos los ciudadanos

usted lleva cinco meses perdiendo el tiempo usted y su gobierno

perdiendo el tiempo lo que hará upyd a partir de ahora lo que seguirá haciendo upyd a partir de ahora es seguir trabajando y seguir dando lo mejor de nosotros mismos

yo quisiera empezar mi intervención con una cuestión de forma porque teniendo en cuenta que la última intervención es la del lehendakari es cuando nos ha anunciado

realmente pone de manifiesto que no busca el debate con los grupos porque no le vamos a poder replicar ni decir qué pensamos de ese plan pero dicho esto

este gobierno necesita dosis de realismo y dosis de realismo no solo este gobierno sino también el grupo que le sustenta señor egibar yo también pensaba que en una comparecencia nos hacía referencia a las intervenciones de otros grupos pero esto también ha cambiado

usted lo único que ha hecho es mirar por el espejo retrovisor decir lo malo que son los demás nos ha puesto de manifiesto la teoría de la conspiración contra el pnv

es que crease que están gobernando que ya no están en la oposición que ya llevan cinco meses gobernando esa es la realidad

que desde un primer momento hemos escuchado actitudes y sobre todo declaraciones que nos hacían

que este gobierno era un gobierno fuerte que tenía las ideas claras y que sabía lo que quería hacer

no contemplamos un escenario de no presupuesto esas declaraciones lo que han puesto de manifiesto es que no era un gobierno fuerte sino que esa fortaleza lo que escondía era prepotencia arrogancia y esa falta de realismo de estar en una situación de minoría lo que les estamos pidiendo señor lehendakari es liderazgo

yo le decía en mi primera intervención que usted lo que no puede hacer es esconderse en su escaño

no se puede ir a bruselas porque nos parece una irresponsabilidad usted debería haber estado al frente de esas negociaciones si realmente quería tener un presupuesto

que no somos como el resto de españa que nuestros indicadores dicen que no somos como el resto de españa me puede usted decir cuánto van a durar esos mejores indicadores con un gobierno en minoría esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos y ustedes especialmente trataron de engañarnos diciendo que fueron a bruselas para buscar la relajación del déficit

esos fueron las primeras declaraciones que hicieron pero cuando vieron que aquello no se podía sostener es cuando hablaron realmente de lo que había de una retirada del presupuesto

conscientes señor lehendakari de que gobernar hoy en estas circunstancias es muy difícil

por propia experiencia se pasa mal pero es que los gobernantes

tiene un problema y es que hoy nadie quiere sacarse la foto con un gobierno por eso usted tiene que poner especial interés

a otros gobiernos que tienen mayoría absoluta la foto no se la quiere sacar nadie se quedan en solitario pero tienen mayoría absoluta y afrontan su situación pero es que en su caso necesita esa foto necesita ese acuerdo porque si no todo eso que usted nos ha dicho de vamos a vamos a vamos a se convertirá en fuimos a fuimos a fuimos a

por tanto les pedimos que afronten esa situación que afronten que hay un desgaste y que el desgaste en este momento para los gobiernos es por acción y también por omisión y de ahí viene la complicación unos compañeros de viaje que quieran ayudar y que quieran arrimar el hombro en esta situación tan complicada

usted hablaba de la actitud del partido socialista de euskadi cuál pensaban que iba a ser

no pensaba que iba a ser la actitud del partido socialista de euskadi ni la de upyd que ahora dice que no ha sido

en que gracias a ellos no había habido un presupuesto esa es la realidad y yo entiendo que hoy ustedes quieran venir aquí y poner el kilómetro a cero el contador a cero

de acuerdo empiecen pero empiecen de verdad y empiecen a poner encima de la mesa proyectos y propuestas que hagan ver que realmente buscan acuerdos porque oiga es verdad que el lehendakari dice que no hemos venido aquí hoy a hablar de presupuestos que veníamos a hablar

efectivamente pero es que la experiencia de cómo se han llevado a cabo las negociaciones en los presupuestos pone de manifiesto su incapacidad para llegar a acuerdos es que yo se lo he dicho en mi primera intervención es que daba la imagen de que

bien poco llegar a un acuerdo y que no les importaba además una cosa que la otra esa es la imagen que ha dado y se lo puedo decir porque yo he estado en esas negociaciones todavía estamos esperando el papel y la respuesta de su gobierno a la oferta que

que también son importantes por tanto hoy usted nos ha dicho que citaba seiscientos quince iniciativas

que lo importante es saber con quién cómo las van a sacar adelante porque sino se quedarán para el diario de sesiones pero no llegarán a los ciudadanos que hoy están viendo cómo el gobierno hace victimismo

hacen un diagnóstico de lo malos que están siendo todos con el partido nacionalista vasco pero dónde están los ciudadanos dónde están sus problemas

los ciudadanos están esperando escuchar y hoy el partido popular ha venido aquí

su apoyo a ofrecer ese apoyo en un plan de estabilidad pero también le queremos dejar claro una vez más algo señor lehendakari

ese nuevo status que usted ha puesto encima de la mesa nuevamente

y mucho nos tememos que se conviertan en ese refugio esconder su incapacidad a la hora de gobernar y que cada vez que no les salga bien uno de esos programas uno de esos planes que están poniendo encima de la mesa usted

por ahí sabe que no va a encontrar al partido popular esa es la línea roja

a trabajar en ese plan de estabilidad pidiéndole liderazgo voluntad de acuerdo realismo y un calendario para saber cuándo y cómo va a poner en marcha todas esas propuestas que tanto necesita el país vasco en estos momentos muchas gracias

sí señora presidenta empezaré por contestar algo al represente del partido nacionalista vasco al señor egibar que ha dedicado su intervención

de gobierno al que apoyan sino a criticar a los grupos de la oposición especialmente al partido socialista lo que es

del grupo que apoya al gobierno y usted ha empezado como no podía ser de otra manera por eso que nos decían en la legislatura anterior

nosotros ya dijimos por activa y por pasiva que el programa de gobierno lo conforma en primer lugar el programa electoral con el que firmas el compromiso con los ciudadanos

después el programa con el que te presentas ante este parlamento en el debate de investidura que es el compromiso con los representantes de la

y después con el calendario legislativo claro ustedes parece que no quieren cumplir el programa con el que se presentaron en las elecciones ante la ciudadanía que no quieren cumplir el programa que desgranó aquí el lehendakari en el pleno de investidura que es el compromiso con este parlamento y que por lo tanto presentan otro y mejor que no lo hubieran presentado porque es bastante más genérico más vago que estos dos anteriores esto de que es el

pero esto ha sido una marcha hacía atrás ha sido un viaje hacía atrás segundo

que el gobierno no le dejó hacer porque usted dijo que había sido un fracaso y que le hubiera gustado venir aquí a debatir los presupuestos

esos presupuestos usted elabora la teoría de la conspiración pero esos presupuestos tuvieron cuatro enmiendas de totalidad una por cada grupo de esta cámara

pensar que el grupo de bildu se puso de acuerdo con el grupo del partido popular para la teoría

los presupuestos tuvieron cinco enmiendas a la totalidad una por cada grupo y la suya

y su gobierno retiró sus propios presupuestos cinco enmiendas de totalidad por lo tanto lejos de la teoría de la confabulación y dejen de faltar a la verdad cuando el gobierno anterior acudió al consejo vasco de finanzas sabiendo que no iba a

fue con una previsión de ingresos ochocientos millónes superior para que este nuevo gobierno

y menos obligación de recortar absolutamente nada fueron otros representantes los que impidieron ese cálculo y por responsabilidad este gobierno anterior se abstuvo

porque qué pretendían que nos resignáramos al reparto de los recortes que nos rindiéramos

sin pelear por tener más ingresos para impulsar a la economía

venían con un recorte del cincuenta y nueve por ciento en políticas de empleo y del sesenta y tres en la estrategia de competitividad y del sesenta y siete en las de innovación

para esos recortes no iban a contar ni contarán nunca con el partido

con una cosa que no quisieron asumir pero que luego el propio lehendakari citó a la hora de retirarlos es decir como había posibilidad de flexibilizar el déficit y tener más recursos en qué quedamos

de más ingresos para hacer políticas diferentes lehendakari

que en la forma su intervención hoy aquí es una trampa y un fraude cómo es eso de que nos posicionemos los grupos de esta cámara sobre algo que nos va a contar después

esto qué debate parlamentario es qué respeto a los grupos

es esta forma de utilizar los tiempos qué es eso de no dejarnos posibilidad de posicionarnos de verdad sobre lo que ha venido a proponer hoy aquí

por lo menos en las formas y así lo tengo que reconocer sintiéndolo mucho

que hemos hecho el debate de presupuestos pero es que los presupuestos forman parte de la acción del gobierno y no de la iniciativa del gobierno de la obligación del gobierno

donde aparezcan los impactos de sus políticas públicas

y cuando le décimos le hablamos de la inacción de su gobierno

se viene para gobernar se viene para actuar y usted nos pone como ejemplo algunas cosas

díganos cuál es el resultado de ese interés eso de verdad forma parte de la acción del gobierno y dice un plan de choque contra por el empleo que se ha remitido a ocho

o es que también los agentes sociales tienen culpa de que no se valore suficientemente su plan de gobierno que era por cierto una especie de recorta y pega de partidas que ya había para aparentar un plan

de cosas y además dice dudo que otros puedan presentar un programa tan concreto como el que

otra vez se equivoca es el gobierno el que gobierna y su obligación la suya y no es transferible a otros es la de presentar los planes y las actuaciones es la de buscar los acuerdos para llevarlos

cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad en todo esto que está pasando

todas las cartas sobre la mesa por cierto las del

acreditamos este grupo presentamos lo mismo que estamos defendiendo hoy tiene todas las cartas sobre la mesa y su obligación es tomar la iniciativa es

u otra sino buscar pactos globales sobre el país sobre la sociedad vasca sobre qué euskadi queremos sobre qué modelo social con qué estado del bienestar con qué servicios con qué modelo económico

todas estas cuestiones no son cabos sueltos que se pueden tratar aisladamente forman parte del tejido con el que definimos este país

empléese a fondo en todo no haga de secretario de actas de lo que décimos los demás ni de notario de las dificultades del país gobierne ejerza

que hablamos de todo y de todo a la vez no para buscar acuerdos puntuales para alguna cosita no no de todo porque estamos hablando del país

es porque redistribuimos riqueza y repartimos cargas pero porque tenemos recursos y queremos hablar también de cómo destinamos los recursos en los servicios públicos

está ligado queremos hablar de euskadi y sobre todo de las personas nosotros también de las personas y qué necesitan tome la iniciativa conocen como digo nuestras posiciones y decida su consejero hoy de empleo y asuntos sociales ha dicho que la solución pasa por un acuerdo

es incompatible el partido popular es el abanderado del recorte y de la privatización en toda españa del retroceso de los derechos y del desmantelamiento de los servicios públicos tiene que optar porque ahí nosotros no vamos a estar nunca

qué imagen de país tiene el partido nacionalista si lo único que pretende es ir

a medida que las políticas del estado van creando boquetes con unas políticas cada vez más liberales y cada vez más salvajes

o si realmente quieren dejar de ser peones camineros y empezar a crear una ruta propia y eso es lo que quisiéramos saber y eso es lo que a veces me preguntan en la calle antes de ayer mismo el otro día unas señora en basauri muy amables unas señoras del pnv

se ha entendido mal una vez más muy amables del pnv

muy amables qué ganas de sacar

y me decían y por qué no nos entendemos entre los vascos

y vimos el resultado de la cámara cómo iba a quedar dijimos es el momento de entenderse entre los vascos y me lo dijeron ellas me lo dicen muchas señoras señores

por qué no nos entendemos entre los vascos también amables no yo

y les contesto pues

cuando me entere de qué están hablando igual nos entenderíamos pero no sé de qué hablan ahora en el tema económico realmente sería

sería una falta de responsabilidad no apretar las clavijas al partido del gobierno para hacer otra política económica porque como sigan haciendo esta política nos van a llevar a la desesperanza más

la metáfora del retrovisor pero nosotros miramos al retrovisor para ver la última curva la última curva que han transitado conjuntamente alderdi popularrak eta zuek sozialistak

porque bien que cortaron el acuerdo el único soporte del denominado plan político

que después venía a sustituir a lo que era el programa de gobierno que era un plan político de las dos formaciones políticas

estratégicamente porque también lo decía egiguren no nos conviene aparecer juntos

lo dijo es literal entonces el señor lópez está obviando siempre el año el año clave que es el año del cierre de su legislatura el año en el que precipita su disolución o la disolución de la cámara por qué disuelve usted la cámara

no ha hecho el salto al dos mil trece y decirnos qué es lo que hubiera querido el partido socialista

pero usted no se atreve a presentar el proyecto de presupuestos y disuelve la cámara que esa es la razón no se atreve no cumple con su obligación

no se quiere reflejar porque aquí practicar la política de soy

del estado español del partido socialista que me opongo desde una atalaya institucional a las reformas y recortes de rajoy no puedo combinar la coalición y tampoco me atrevo no me atrevo a traducir este pensamiento

son ficciones por lo tanto miro al retrovisor pero para saber que tenemos la última curva ya superada que afortunadamente está superada

no hay posibilidad de una alternativa pp psoe psoe pp

para muchísimos años digo para muchísimos años desde luego por lo tanto después decía el señor lópez que ya habían hecho la previsión en el consejo vasco de finanzas de que pudiera haber una flexibilización del déficit pero

eso lo conocemos por los medios de comunicación y por lo que ha manifestado determinados lideres sí sí y el viaje

para confirmar en primera línea por las máximas autoridades de europa de que es esa línea de trabajo podía ser considerada pero

si es viable hasta el veintinueve de mayo y con todo en el documento que el lehendakari remite a todas las formaciones políticas existe un compromiso de que en ese supuesto de flexibilización o relajación del déficit un compromiso a acordar aunque no hiciera falta a acordar el destino no de ese mayor ingreso sino de esa posibilidad nuevamente de endeudamiento ese es el compromiso qué es lo que ha ocurrido dicen

tangibles se les lee a determinados lideres y efectivamente no ha habido una confabulación que pasa desde upyd

y eh bildu claro que no pero que entre eh bildu y el partido socialista ha habido o ha existido vamos a denominar una coincidencia en el pensamiento sí coincidencia en el pensamiento de desgastar al pnv

lo que ustedes admiten para gipuzkoa porque

no interesa desgastar a eh bildu porque eso refuerza al pnv lo aplican los dos conjuntamente aquí y la última intervención de la señora mintegui cuando habla de esas señoras amables del pnv

y lo que hemos comprobado es que en el momento en el que en la materia vamos a decir troncal

el punto en el que el partido socialista decide virar a un lado tirar para delante o quedarse

un acercamiento entre las posiciones entre el partido socialista y nosotros dos pasos atrás

o se pospone inicialmente erá condición sine qua non para abordar el debate presupuestos

en el que hay un acercamiento hay una separación ahora

nuevas condiciones revisión del sistema institucional vasco etcétera etcétera

que no pase por el gobierno de coalición para hablar de lo que les interesa

contemplan algún escenario de colaboración parlamentaria que no pase por el gobierno de coalición porque las primeras reuniones

entonces ahora sabemos que contemplan algún escenario que no pasa por el gobierno de coalición pero que podemos llegar a acuerdos

el partido nacionalista vasco hori da zure perzepzioa política liberal salvaje

zuk esan duzu que lo importante es marcar el camino la ruta propia

usted me insistía en que usted no participa del bloqueo que se ha mencionado aquí en las intervenciones parlamentarias sin embargo

le ha recordado también sus propias palabras en relación a lo que es su protagonismo

como consecuencia de una actitud de bloqueo acompañada por otras formaciones políticas me puede decir usted señor maneiro de cuáles de las tres cuestiones de las que ha planteado usted el redimensionamiento del sector público la fiscalidad y lo que es la arquitectura institucional de cuáles de esas tres no hay un debate en este parlamento en estos momentos o un debate entre el lehendakari y gobierno vasco y grupos parlamentarios porque le recuerdo que sobre el redimensionamiento del sector público ha sido

un plan de redimensionamiento del sector público que luego ha tenido también su reflejo en un pleno monográfico en esta cámara en relación

sobre el que he insistido en mi intervención en la presentación de nuestro programa de gobierno del programa de gobierno de este gobierno vasco y sobre fiscalidad me puede decir usted si no ha sido

a los grupos políticos ha presentado también el camino para abordar el debate sobre la fiscalidad

en un pleno monográfico no se ha decidido también algún acuerdo la semana pasada sobre esta cuestión en el pleno del parlamento vasco

o no hay un planteamiento de una ponencia parlamentaria para que aborde sobre esa cuestión son los grupos parlamentarios por lo tanto quienes están representados en esta cámara quienes participarán de esos grupos de trabajo de esas ponencia y en todo caso también quien en su caso

dé una respuesta a lo que es el planteamiento del documento de bases elaborado por este lehendakari y su gobierno y presentado a los lideres de los grupos parlamentarios

para sus aportaciones donde se incluye el tema de la fiscalidad señora quiroga me ha planteado su queja será a hora al final de mis intervenciones cuando plantee la propuesta concreta pero es que es la propuesta también que viene

sobre el que el partido popular tampoco a mi me ha presentado ninguna respuesta como complemento a lo que fue

yo creo sinceramente que usted ha confundido lo que fue la motivación de mi viaje a bruselas usted se cree que

con el presidente de la comisión europea señor durao barroso

con el comisario de competencia señor almunia

yo voy como lehendakari a plantearle la necesidad de la relajación del déficit

no son competentes para ello que me digan verdaderamente si hay

se cree realmente que yo he ido a hablar de estas cuestiones solamente con estas personas yo creo lo que realmente le molesta a usted y le molesta al partido popular es

haya podido entrevistarse con el presidente de la comisión europea y con el presidente del consejo europeo

para tratar de las cuestiones que también afectan al entramado social económico de la comunidad autónoma del país vasco y que un lehendakari haya planteado también a la comisaria de asuntos internos una reflexión

pero en cualquier caso termina usted haciendo una

usted se cree realmente que yo no soy consciente del desgaste político institucional que yo como lehendakari de este gobierno pueda estar

a pesar de presentar un fondo de reactivación económica un plan de reactivación económica un fondo de financiación del circulante un plan de pymes un plan de empleo

un plan de reactivación económica y de choque por el empleo de generación de empleo

a pesar de haber traído aquí un proyecto de ley aprobado en cámara como consecuencia de una carencia del gobierno anterior en relación a la paga extra de los funcionarios a pesar de todo eso usted se cree que yo no estoy acusando como lehendakari del gobierno vasco el desgaste

desde el primer día ni siquiera con el planteamiento de los cien días

o cortesía política institucional para este gobierno realmente soy consciente desde el día doce de diciembre trece de diciembre mejor dicho que soy lehendakari de un gobierno que tiene atender a toda la sociedad y señora mintegi lo dije en el debate de investidura y se lo digo hoy nuevamente

a las señoras estas tan amables del pnv con las que se encontró usted en basauri para mí vascos son tanto los del partido nacionalista vasco eh bildu como también partido popular

usted se cree señora quiroga que un lehendakari de un gobierno con un apoyo de veintisiete parlamentarios

autonómicas y después posteriormente en otras rondas otros grupos políticos han decidido

no comprometerse con la realidad porque no quisieran estar en este pellejo

y usted señora quiroga sabe que en cuanto a lo que pueda ser un gobierno con una mayoría suficiente absoluta

para alcanzar esa mayoría absoluta con el partido nacionalista vasco por eso es por lo que estamos planteando por todo ese cúmulo de circunstancias es por lo que estamos planteando señora quiroga acuerdos de estabilidad desde el primer momento desde el día de las elecciones

ante lo cual insisto está muy bien ahora durante cuatro o cinco meses estar en los medios de comunicación criticando al gobierno porque es lo que corresponde y además es fácil en esta situación de un gobierno en minoría pero al mismo tiempo ocultando lo que es su no disposición a asumir una realidad

sino que era ya anteriormente cuando lo planteamos como acuerdo de estabilidad desde el partido nacionalista vasco a todos los grupos políticos con representación en esta cámara señor lópez

denunciaba la trampa en la gestión de los tiempos

por haber ocultado el debate ya señor lópez pero es que lo que le voy a plantear es

a que conteste usted a lo que yo mismo a usted le propuse en el debate del proyecto de presupuestos con el documento de bases y que todavía hoy sigo esperando su respuesta todavía hoy sigo esperando señor lópez su respuesta lo único que me he encontrado es con una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos y ninguna enmienda parcial por parte del grupo socialista

señor lópez y no me termine usted su intervención diciendo que no está dispuesto usted a un acuerdo de estabilidad con el partido popular señor lópez si es su secretario general del partido socialista obrero español el señor pérez rubalcaba el que le está ofreciendo al señor rajoy en estos momentos un pacto de estado

que ha estado como lehendakari en un gobierno apoyado por el partido popular

con el apoyo del partido popular decir que no va a llegar a ningún acuerdo que nosotros ofrezcamos de estabilidad

porque usted plantea lo que es la demanda de la ciudadanía cómo plantea usted que no va a llegar a ningún acuerdo en el que esté el partido popular cuando su propio secretario general

de tantas incongruencias en todo caso

no sobre una propuesta de acuerdo de estabilidad sino sobre el programa de gobierno

donde iban los derroteros en las primeras intervenciones es por lo que he decidido hacer esta última intervención con la propuesta concreta en este último tracto de mi intervención

hartu behar ditugun oinarrizko erabakiak adostasunaren bidetik hartzeko me van a permitir por lo tanto centrar esta última intervención en concretar la propuesta que he realizado

una estabilidad asentada en un suelo económico que se ha reclamado en intervenciones durante esta mañana en un suelo económico que permita reactivar

la economía vasca y generar nuevas oportunidades de empleo una propuesta de estabilidad que me corresponde concretar y que voy a basar en seis compromisos concretos un primer compromiso para acordar la reforma fiscal incluyendo la reforma del irpf a través del consenso en los nuevos coeficientes y tarifas

incluyendo la reforma del impuesto de sociedades manteniendo los incentivos dinamizadores de la actividad y el empleo revisando los regímenes especiales del impuesto

incluyendo la concertación de nuevas figuras tributarias en los ámbitos de actividades de juego los depósitos de las entidades de crédito y el ámbito energético esta reforma está orientada por el objetivo de garantizar la justicia social e impulsar la actividad y el empleo la reforma en todo caso debe otorgar certidumbre y contribuir a garantizar la suficiencia financiera para la sostenibilidad de las políticas sociales un segundo compromiso

incluyendo la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra el fraude incluyendo la prevención y persecución de las distintas vías de elusión optimizando los recursos

incluyendo la permanente actualización de las distintas bases de datos incluyendo también la creación de una comisión de lucha contra el fraude como órgano de carácter técnico especializado

para crear un fondo extraordinario de reactivación económica un programa específico de inversión para proyectos orientados al mantenimiento y creación de empleo la dotación de este programa específico será de doscientos millónes de euros para el presente año se planteará

en el objetivo de déficit estos recursos adicionales se destinarán a las áreas de investigación y desarrollo política industrial e inversión en infraestructuras un cuarto compromiso con la creación

por el empleo dotado con cuarenta millónes de euros este fondo se destinará a incentivar la contratación de personas desempleadas de larga duración la contratación de personas beneficiarias de la renta de garantía de ingresos así como a facilitar una primera experiencia laboral

un quinto compromiso con la puesta en marcha de un plan de apoyo a la actividad emprendedora orientado tanto a las personas autónomas y profesionales como a la pequeña empresa este plan estará orientado a la creación de mejores condiciones de competitividad y la generación de nuevas oportunidades de empleo

y un sexto compromiso con la reforma y con la reestructuración del sector público vasco un plan que haga efectivo el objetivo del redimensionamiento del sector y su adecuación a las disponibilidades económicas de las instituciones públicas este compromiso se adoptará a lo largo de este segundo semestre del año e incluirá en todo caso la reducción del sector en un veinticinco por ciento a lo largo de la presente legislatura son seis compromisos concretos para acordar la estabilidad

para impulsar la reactivación y la creación de empleo creo sinceramente que en estos compromisos podemos encontrar una base sólida para el acuerdo una base para unir nuestros esfuerzos institucionales y políticos para demostrar a la sociedad vasca que tenemos capacidad de superar las desavenencias y actuar con unidad

y generar empleo convocaré en los próximos días por una parte en ajuria enea conjuntamente a los máximos representantes institucionales y por otra parte también conjuntamente a los líderes políticos para plantear un acuerdo para la estabilidad por la reactivación económica

creo sinceramente que este acuerdo de estabilidad es la señal de confianza que nos está demandando la sociedad y tengo por último la convicción de que este acuerdo por sí mismo va a permitir acelerar el tránsito de la recesión al crecimiento

para poder contarnos aquí en europa y en el mundo es poder vivir la cultura como un espacio de debate y replanteamiento social europa es el pretexto para confrontar y generar ideas a través de la cultura kultura zentzu zabalean

proyectos inclusivos gestión político técnica generación de creación procesos creativos no de exhibición recuperar la plaza pública a través de procesos comunitarios

desarrollar valores y delegar trabajar en creatividad para la educación poner en valor la creación erakundeen enpresen eta

kontsumo edo exhibizio ereduari aurre egiten dio se trata de pasar de ciudad y país exhibición a ciudad y país creación

es activismo cultural acción activismo social redes humanas creación y generación donde la voluntad política

es unir política y cultura no es producción es activismo unión de activismo civil y protagonismo institucional pero dejando hacer

eta herrigintzari egiten utziz generando así una cultura no asistencial es cambiar y compartir miradas vivir encontrarse y hablar es un encuentro cultural reprensando europa es un efecto transformador que mira la empleo

y a las lenguas minorizadas es creación de redes que traen consigo una articulación territorial no se ha inventado nada se trata de recoger lo que ya hay y darle valor

disculpas por el tono y por las posibles toses porque estoy en un proceso gripal y no solo muy brevemente

el voto favorable del partido popular al acuerdo a la enmienda de transacción al que han llegado los grupos

y nacionalistas vascos por lo tanto tampoco parece que haya mucho debate en algo que afortunadamente coincidimos

quizás no coincidimos tanto en algunos de los detalles en el relato o en la enumeración de lo que debe de significar la capitalidad cultural donostia dos mil dieciséis

y llegando a entendimientos en el futuro por el bien del proyecto no solo estamos de verdad ante un proyecto de carácter cultural que fundamentalmente es un proyecto de carácter cultural

y también posicionar el conjunto de españa porque no hay que olvidar que san sebastián va a representar culturalmente a españa este año el año dos mil dieciséis sino que es un proyecto estratégico que nos debe posicionar también

mucho que compartir y mucho que enseñar de nuestra cultura pero también de el entendimiento de la cultura como algo que

que acerca a los territorios y que desde luego nos hace ser mejores

en relación con el pasado pero con una proyección razonable también con respecto al futuro

san sebastián dos mil dieciséis hay que recordar que se redactó en un contexto económico determinado también

el ayuntamiento de san sebastián la diputación el propio gobierno vasco y también el ministerio de educación y cultura contaba con unos recursos económicos determinados esperemos que en el año dos mil dieciséis los recursos económicos se parezcan más

no sería bueno también que lo tuviéramos en cuenta

las circunstancias han cambiado eso me lleva a

y es que esta situación económica que a todas las administraciones les genera objetivamente una situación incómoda con respecto a su aportación al proyecto

no se convierta en una arma arrojadiza política no hagamos partidismo

y que habida cuenta de lo que hemos oído aquí hasta el momento y lo que vamos a oír el resto de intervenciones

no convirtamos algo positivo algo que es un potencial para nuestra tierra

en un ejercicio de discusión política derivado de cuestiones de orden política por intentar aprovechar

o no convirtamos tampoco este proyecto positivo en un problema

económica complicada que obliga a las administraciones a hacer un esfuerzo suplementario para su apoyo

señora presidenta diciendo que estamos

a través de la cultura eso nos obliga a todos

hacer un esfuerzo de entender que eso es así y de entender que la cultura es universal y solo puede ser universal

mucho que contar tenemos mucho que compartir pero no compartamos por favor la cultura como un elemento de separación

señorías buenos días en la carta institucional de presentación del proyecto cultura para la convivencia que permitió a donostia san sebastián

la diputación foral de gipuzkoa y el gobierno vasco manifestaban que en esta europa en construcción en la que estamos atravesando momentos difíciles derivados de la crisis económica y sus consecuencias sociales nada podríamos hacer sin una ciudadanía activa responsable y solidaria y sin la fuerza

estas olas de energía ciudadana que han dado nombre y han sido el alma de nuestra candidatura

convicción y entusiasmo para generar una ilusión colectiva que nos permita trabajar juntos en un mismo proyecto cultural superando odios y diferencias

en favor de la capitalidad europea de la cultura san sebastián dos mil dieciséis este proyecto es una gran oportunidad y al mismo tiempo un desafío

tiene que contribuir a la construcción de ese horizonte de reconciliación cívica renovación y transformación cultural de san sebastián

y del país vasco que queremos compartir con españa y con europa hace un año que el consejo de ministros de cultura de la unión europea aprobó la decisión definitiva

para la celebración de este evento internacional en el año dos mil dieciséis el programa que nos comprometimos a desarrollar ante el jurado internacional de selección de esa capitalidad se articulaba fundamentalmente sobre el concepto de la cultura basada en al potencia creativa de las personas y en su capacidad para activar

espacios de convivencia donde el diálogo pueda hacerse efectivo se pretende promover la creación de lugares donde nuestras múltiples identidades

lugares donde se respeten y potencien la diversidad cultural

para conseguir la igualdad y la participación de todos con el proyecto cultura para la convivencia se pretende recuperar el efecto social de la cultura y la educación y potenciar el valor de la creatividad como medio para consolidad la concordia así como para contribuir a la mejora de la convivencia en todo el continente europeo este proyecto es fruto de un proceso colaborativo abierto y contrastado que ha sido posible gracias a la implicación de muchísimas personas de muchísimos colectivos de muchísimas organizaciones e instituciones de nuestra sociedad

no se agota ese año dos mil dieciséis será un año en el que el proyecto

tendrá su máxima expansión pero también tendrá continuidad de otra forma seguramente pero con vinculación a la capitalidad europea hasta el año dos mil veinte

para san sebastián para gipuzkoa para euskadi y para españa se convierte también en un proyecto estratégico y que como tal requiere de liderazgo

y más allá de cualquier polémica en las instancias judiciales es el momento en el que donostia san sebastián que representa a gipuzkoa
que representa a euskadi mesedez isilik a españa y a europa pueda contar realmente

con el apoyo y la ayuda en este caso del gobierno vasco como patrono fundador somos conscientes de las limitaciones presupuestarias pero hablamos de un evento internacional que se celebrará en el año dos mil dieciséis y la capital europea de la cultura debe ser un elemento de motivación colectiva y de ilusión para un conjunto de organismos culturales y de gentes del mundo de la cultura y más allá de ese mundo de la cultura en el caso de euskadi de gipuzkoa y de donostia

y el apoyo cultural que el gobierno vasco debe realizar a nuestro modo de ver con claridad y sin titubeos un apoyo económico financiero ajustada a las posibilidades presupuestarias

ambicioso y realista porque de un presupuesto estimativo de noventa millónes de euros se pasó a uno de setenta y dos millónes de euros y parece que vamos camino de una segunda reforma por eso los socialistas señora consejera requerimos del gobierno vasco como ya lo hemos hecho ante el ministerio de educación cultura y deporte un compromiso económico claro para un proyecto que tiene que ir de menos a más

contar exclusivamente con la misma aportación del año pasado para este año ya dos mil trece por eso solicitamos un compromiso de aportación equitativa y un consenso en las aportaciones de los próximos ejercicios para los cuatro patronos fundadores

tan importante como el apoyo económico resulta para la fundación donostia dos mil dieciséis la colaboración técnica

como centros artísticos unidades de producción etcétera de que disponen tanto el gobierno vasco como el gobierno del estado los socialistas vascos

puede tener puntos débiles y adolecer de falta de liderazgo

debe comprometerse y hacer suyo el proyecto de una de sus capitales el gobierno vasco no puede incentivar o hacerse cómplice de añadir un nuevo agravio entre las tres grandes ciudades de euskadi cuando este proyecto cuenta con su apoyo

ante una oportunidad única para todos si el gobierno vasco de verdad se cree el proyecto y lo comparte su apuesta debe ser clara y decidida sin titubeos y con liderazgo y si no lo es que lo diga también claramente

exclusivamente de postal las ciudades tienen la obligación de proponer salidas a la crisis

si tienen un tejido económico productivo y social más o menos sólido y más o menos cohesionado y si no dejan escapar que no sea este el caso oportunidades por las que han luchado con ahínco y con pasión

el caso de donostia la apuesta de san sebastián como capital europea de la cultura no pretende ser un listado de actividades y programas a desarrollar desde el uno de enero del dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de ese mismo año los comisarios europeos quedaron impactados por el proyecto cultural presentado por san sebastián

por los valores y la forma de entender la cultura que exponía y porque contaba con el entusiasmo de una ciudadanía volcada en un proyecto

nos alejamos de aquella capitalidad concebida y algo todavía peor vamos perdiendo entusiasmo ciudadano estamos todavía a tiempo de poner remedio

un grave error en un momento clave para el devenir de san sebastián recuperemos con hechos la puesta en valor y la movilización de la energía vital

y el espíritu crítico para llevar a cabo un proceso de transformación social y cultural muchos donostiarras yo entre ellos

ese título de capitalidad cultural donostia san sebastián dos mil dieciséis por la gran oportunidad histórica que se abría ante nosotros

no solo para gipuzkoa no solo para euskadi también para españa y para europa yo solamente espero que nunca tengamos que lamentarnos de haber dejado escapar y desaprovechar esta oportunidad única y excepcional

a los grupos que hemos firmado la enmienda y aquellos que van a apoyar dicha enmienda transaccional porque de lo que se trata es de ir juntos por esta senda que se ha abierto

sí gracias presidenta estas son las razones por las cuales donostia san sebastián presentó su candidatura

oficiales que en su momento se expusieron se decía porque apostamos por la cultura y la educación en valores como instrumentos de cambio y transformación social para hacer frente al gran reto actual de europa de sus ciudades de todos y de todas

su convivencia porque es una oportunidad para que la creatividad y la innovación regeneren y promuevan sinergias entre sectores que habitualmente no se crucen

donosti san sebastián como laboratorio de experiencias que permitirá revisar nuestros códigos y políticas culturales porque queremos que el propio proceso sea el objetivo iniciar el viaje del río a la bahía en la que denominamos un proceso se decía así

reaccionan de forma creciente hasta alcanzar su punto álgido en dos mil dieciséis para disolverse después y propiciar un efecto curativo o transformador

porque generará los impactos interculturales y socioeconómicos que supone celebrar un evento de dimensiones internacionales obviamente nosotros compartimos

al parecer hay apoyo unánime de los grupos presentes en esta cámara en dar nuestro apoyo a donostia dos mil dieciséis se habla

de territorio y de país y siendo esto cierto nosotros esperamos que sea un proyecto cultural pensado para los ciudadanos

un servidor como donostiarra como vasco como español pero sobre todo como ciudadano y especialmente como habitante de san sebastián espero que sea un éxito qué sería un éxito para nosotros pues que el proyecto tenga contenido que no sea humo o palabras bonitas sino que tenga repercusión positiva en la sociedad

que tenga repercusión práctica que sirva para internacionalizar la ciudad y traer turismo que sirva o suponga un impulso para la dotación cultural de san sebastián que sirva para dar un empujón a determinadas infraestructuras que siguen siendo necesarias en la ciudad y que siguen siendo pospuestas

para impulsar la actividad cultural y la cultura que sirva para mejorar la convivencia y fomentar la pluralidad que sirva para hacernos a todos mejores que sirva para hacernos más críticos y más libres como ciudadanos que sirva para impulsar la creatividad de las personas

que este proceso y este proyecto habrá sido un éxito

dicho esto tenemos que decir también que nosotros estamos seriamente preocupados

san sebastián la gobierna bildu con todo lo que eso significa y nosotros estamos ciertamente preocupados por la falta de liderazgo que está mostrando bildu en la defensa e impulso de este proyecto estamos ciertamente preocupados por la labor que está realizando en el día a día y también en lo relacionado con este proyecto el gobierno municipal de bildu estamos seriamente preocupados porque bildu nos desgobierna en san sebastián ciertamente no cree en europa como la entendemos nosotros porque bildu no cree en la cultura como la entendemos nosotros

como la entendemos nosotros y porque en definitiva bildu no cree en la pluralidad y bildu no cree en la tolerancia en definitiva

no cree en todo aquello que debería ser la base del proyecto y en todo aquello que debería fomentar y dicho esto también tengo que decir que en todo caso debemos ser los ciudadanos donostiarras guipuzcoanos vascos especialmente

y hagamos posible este proyecto y que pueda tener éxito ciertamente la capitalidad cultural de san sebastián fue un regalo

que un regalo aún mayor y una noticia aún mejor se producirá cuando deje de gobernarnos bildu nosotros esperamos que pueda ser cuanto antes y que bildu

en san sebastián creo que sería seguramente el mejor paso para defender todos los valores que implica ser capital europea

apoyo unánime a donostia dos mil dieciséis nosotros esperamos que tenga el mayor éxito posible

en última instancia sirva para lo que debe servir no para vender humo si no sobre todo para garantizar

más cultura mejor cultura para el conjunto de los ciudadanos donostiarras guipuzcoanos vascos españoles y europeos

eskerrik asko el partido nacionalista vasco ha trabajado trabaja y trabajará

maneiro por alusión has dicho que bildu no quiere que bildu no se compromete que bildu no está por la cultura que pla que pla que pla pero por el momento son las dos únicas instituciones que han cumplido el compromiso de la

plurianual simplemente aclarar eso

el proyecto de capital europea de cultura requiere de tres premisas para su éxito liderazgo apoyo

y es incuestionable para los socialistas vascos que para resultar elegida san sebastián contó con el liderazgo político necesario con la cohesión de las diversas fuerzas políticas con el apoyo interinstitucional y con un movimiento social y de participación ciudadana

y así se construyó un proyecto cultural con el que se consiguió un título que le otorgó un jurado internacional que valorando positivamente a otras ciudades como burgos segovia las palmas de gran canaria y zaragoza considero en cambio de más valor

un instrumento al servicio de la convivencia entre las personas por encima de cualquier tipo de diferencia social religiosa ideológica económica identitaria o lingüística y en indudable que la cultura también tiene una dimensión económica una dimensión de motivación humana

y en los creadores que al menos esta candidatura pretende potenciar por tanto debemos de ser capaces entre todos porque aquí nadie resulta prescindible

para el desarrollo adecuado de la capitalidad europea de la cultura donostia dos mil dieciséis por ser una oportunidad única para activar toda la energía y la creatividad ciudadana para contribuir desde la realidad y la esperanza de futuro del país vasco

el hoy y el mañana cercano a europa haciendo valer el eslogan interinstitucional de cultura transformadora para una década de convivencia

y plurianual hasta el año dos mil veinte que permita el desarrollo adecuado del proyecto no puede ser que superada con éxito la selección de la candidatura

para darle la cobertura económica que requiere un proyecto de esta envergadura tenemos la responsabilidad de no malgastar las energías ciudadanas

espero de verdad que seamos capaces de evitar la resignación ante los malos tiempos económicos en un proyecto de este calado que como decía en mi primera intervención

para san sebastián gipuzkoa euskadi y españa y también para el futuro de europa muchas gracias eskerrik asko corcuera

erdaraz actualmente el patronato de la fundación donostia dos mil dieciséis

señorías ess bilbao no merece una posición de incertidumbre

de todas las fuerzas políticas representadas en este parlamento porque es una importante infraestructura que nos va a ayudar nos está ayudando ya

desde el inicio de su andadura en la presente fase

ess bilbao ha identificado como una de sus prioridades el dotarse de capacidades técnicas y humanas que permitan

empeñado en desarrollar su actividad en asuntos relativos a la provisión de equipamiento

científicas es verificable ahora

ha desarrollado equipamientos y equipos humanos que a día de hoy prestan servicio destacado a todas cuantas entidades han manifestado interés en recabar su apoyo

ess bilbao mantiene actividades relevantes tanto en cuanto a desarrollos científico técnicos propios así como en apoyo al sector

ya desde los primeros meses de dos mil diez se procedió a la dotación de recursos técnicos necesarios para la infraestructura

en la manufactura de equipamiento de alto valor añadido se desarrollaron

en el polígono industrial de jundiz e importantes desarrollos

micromanufactura modelado neutrónico dinámica de fluidos

convertidores moduladores ingeniería de blancos sistema de transporte y detectores de neutrones estudios de estanqueidad

es decir capacidades que nos han permitido participar

internacionales para proveer de estructuras de experimentación a gran escala a empresas e instituciones que a su vez participan en tales infraestructuras como iter isis cern ingn ill

esto en relación a algunas de las cosas desarrolladas no tenemos tiempo para hablar de todas y quedan en el futuro enormes capacidades en las que podemos entrar entre ellas el desarrollo que va hacer iter de algunos motores y también

posibilidades claras de ampliar en los próximos años

esos apoyos industriales que el consorcio viene desarrollando sirviendo de red fundamental para la experimentación en laboratorio y prototipados a la industria vasca

el proyecto de esta proposición no de ley es el de buscar fundamentalmente la activación de parlamento y gobiernos en respaldo

el apoyo de los grupos parlamentarios de esta cámara al proyecto ess bilbao y el de orientar con determinación el próximo futuro instando a los órganos de gobierno del consejo rector de ess bilbao a clarificar

el próximo futuro y a actuarlo se trata como sabemos señorías de un proyecto de alta importancia estratégica que tiene que ver con el impulso que se desea conseguir

y la instrumentación científica de muy alto valor añadido es un proyecto muy complejo porque es un proyecto de investigación es un proyecto de ciencia no copia no

a este proyecto no se le pueden aplicar las categorías al uso hay que aplicarle la demanda constante en cuanto a requerimientos de calidad

ess bilbao es la primera instalación científica técnico singular que se construye

según el asesoramiento científico del que disponemos el proyecto es correcto desde el punto de vista del desarrollo de tecnologías de aceleración y de neutrones el equipo de trabajo es de calidad la dimensión propuesta para la instalación es adecuada al presupuesto y a las instalaciones ya existentes en europa

y en el resto del mundo ess bilbao mantiene además

diseño construcción y previsiones futuras el porte de una infraestructura científica independiente una en palabras del propio report stand

lo que significa que no se ha construido no se ha concebido como

de otra instalación existente en otro lado puede servir también a esa instalación pero está concebida

para dar servicio por sí misma para tener sentido por sí misma ess bilbao tiene personalidad jurídica propia configura como sabemos un consorcio entre la

a partes iguales componiendo sus decisiones en el seno del consejo rector

un voto está planeada para una inversión de ciento ochenta millónes de euros noventa millónes de euros por cada una de las dos administraciones durante un período de financiación

en términos del informe elaborado por la comisión asesora científica y entregado a la presidencia del consejo rector

infraestructura ocuparía un lugar de utilidad entre otras existentes en europa y en el resto del mundo sería una infraestructura de tamaño medio más pequeña que isis en el reino unido o que

en estados unidos pero mayor que otras como

el concepto de la infraestructura prevista es correcto seguimos a los científicos

seleccionada para acelerar partículas y producir neutrones es la apropiada las tecnologías son de última generación innovadoras y capaces de conseguir buenos resultados las elegidas para los elementos del acelerador son las adecuadas se han hecho muchas cosas

se han establecido colaboraciones con las mejores infraestructuras del mundo como el

además el proyecto ha sido estructurado de tal manera que permite adquirir adaptar y desarrollar tecnologías al mismo tiempo que se forman en técnicas de aceleración los investigadores y científicos que trabajan en el equipo todo se ha realizado en una estrecha

el equipo de trabajo está bien cualificado y comprometido con el proyecto trabaja como saben sus señorías

que ha sido capaz de conseguir importantes colaboraciones y bajo la dirección ejecutiva del doctor cuya incorporación al proyecto ahora hace año y medio de importante impulso además consta o cuenta con una importante comisión asesora científica compuesta por cinco personas

hay dos asuntos que quiero destacar especialmente más allá del desarrollo científico del blanco y otras utilidades

a la formación de un equipo de especialistas que hoy no tiene parangón en técnicas de aceleración la segunda cuestión

mi intervención sin embargo he de decir que traerlo hasta aquí no ha estado exento de dificultades

creo poder afirmar con alguna experiencia que ess bilbao es una criatura delicada que podía haber ido al traste dos o tres veces ya

y que ha sobrevivido gracias solo a un extremo cuidado a una gran paciencia y a mucha determinación

pero sobre todo que haya determinación para clarificar el próximo futuro y por eso

que afortunadamente cuenta con el apoyo de la cámara una enmienda de transacción que quiere evitar la inacción que busca la activación en relación a ess bilbao ess bilbao no va a avanzar por una mera inercia

cuidando esa infraestructura por eso nuestra enmienda de transacción consta de seis puntos que explicitan primero un respaldo de esta cámara a la fuente de neutrones por espalación

que además reclama al gobierno de españa el cumplimiento de sus obligaciones financieras en relación al dos mil doce y al dos mil trece respecto a esta infraestructura que insta a clarificar los esfuerzos que han de realizarse para la instalación autóctona y los esfuerzos que han de realizarse

que además afirma que tiene un equipo

y además viene a reconocer que el papel de la universidad ha de ser estimulado porque es importante la relación entra la infraestructura

finalmente concluye con una petición una exposición de los señores parlamentarios allí mismo en el parque tecnológico de zamudio donde se encuentra principalmente

principal para que conozcamos de primera mano como está a día de hoy el proyecto

a ver sido ese proyecto de construcción que está preparado para ser licitado y que necesita ser licitado para lo cual es preciso desbloquear el tema de los terrenos de la parcela

desde dos mil doce y presto y dispuesto para salir a licitación señorías es muy importante que esta enmienda de transacción sirva de respaldo a esta importante infraestructura y que trabajemos activamente todos juntos

está claro que servirá de muchísimo investigación y desarrollo no solamente para nuestra ciencia
sino también para nuestra industria nada más muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

mi grupo siempre ha apostado por esta infraestructura se ha demostrado en la anterior legislatura y lo seguirá haciendo conocemos este tema vuelvo a decir que en la noveno legislatura ya nos involucramos en el desarrollo en el reto de ess bilbao

inicialmente en la octava legislatura donde todo esto también empezó a andar y lo conocemos

hemos visitado sus instalaciones hemos aprobado resoluciones hemos puesto trabajo

hemos avanzado bastante en esta materia nosotros pensamos que ese esfuerzo no debe desaparecer yo creo que

sido mejor primero responder

y luego haber hecho efectiva con posterioridad una declaración parlamentaria a

haberlo hecho de una manera un poco más concreta conociendo algunos de los extremos que de momento tampoco tenemos muy claros y que queremos conocer es decir el punto seis de la enmienda de transacción que ustedes han firmado y que nosotros apoyaremos

a los grupos parlamentarios del proyecto básico del ess bilbao validado por la comisión asesora científica y aprobado por el consejo rector en el que se abordan y detallan los objetivos generales y específicos la memoria técnica planos

estas cuestiones y algunas más en relación con el funcionamiento

declaración quizá mejor ubicada pero en cualquier caso

meses es un tema importante una infraestructura de futuro

tecnológicas y científicas sobre el papel ess bilbao llevaba camino de constituirse en la referencia europea

instrumentación avanzada en ciencias de aceleradores y blancos con una novedosa aproximación científico e industrial y eso con un impresionante apoyo

en el tejido tecnológico vasco eso también lo hemos visto lo conocemos nos lo han enseñado y eso también hay que desarrollarlo

debe de llevar todavía camino de constituirse en esa referencia europea en relación con eso nosotros cómo no seguiremos apoyando y valorando esa posibilidad está claro que las inversiones inyectadas en proyectos de ciencia

luego multiplican sus resultados económicos los ejemplos ahí están son muchos en el mundo en relación con este tipo de tecnologías el tevatron

algunos los impactos económicos en relación con treinta años de funcionamiento se calculan

en cifras que a veces marean un poco pero que son positivas que se demuestran que son así incluso en generación

pero es parecido o por lo menos tiene que seguir esa línea de seguir generando a propuesta y a raíz de inversiones públicas de inversiones económicas impactos económicos importantes parece que tenemos las condiciones para que eso siga así está claro que no es fácil asentar

pero las bases están ahí y la apuesta de futuro de este tipo de tecnologías va a ser buena para euskadi y

voluntarismo no es algo que podamos intuir no no lo estamos viendo ya y en ese sentido yo creo que hay que seguir profundizando además se ha convertido se ha desarrollado en el marco de un gran acuerdo porque aquí grandes ess bilbao junto

el momento y en ese sentido la industria de la ciencia las industrias tecnológicas la de la investigación en este tiempo de colaboración en más de un año de colaboración

obtenidos en muchas disciplinas resultados científicos colaboración de científicos intercambio de investigadores la asociación esa de la industria de la ciencia vasca de tecnalia en el proceso de desarrollo

ahí están los resultados industriales mejor capacitación industrial de las empresas nuevos productos subcontratas disponibilidad de

a la fabricación bueno eso se está demostrando eso lo hemos visto nosotros también hay resultados positivos en aspectos formativos hay muchas tesis doctorales aprobadas en marcha que se valoran sobre esta cuestión es decir eso lo estamos viendo

de la universidad congresos cursos de formación formación de personal

hay que preparación para la física de partículas bueno todos lo estamos

involucrar perfectamente ahí y hay un campo un campo que además económicamente

resultados económicos más resultados en relación con la generación de referencias y la posición de nuestras empresas

ahí están las cuestiones está bien claro que efectivamente esto es un paso más esta declaración es un impulso trataremos de que eso sea así nosotros votaremos a favor y

de la próxima reunión que tengamos con los responsables del ess también

ha estado ha tenido dificultades incluso de gestión incluso de gestión interna algunas que han llegado incluso al toque del pequeño desprestigio en relación con algunas actitudes personales un poco

y seguiremos apostando por la infraestructura muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den etxeberria jaunak dauka hitza

empiezo por agradecer a sus señorías el apoyo prestado me parece

de gran importancia en este momento porque obviamente la proposición no de ley trae causa de una gran preocupación que se suscitó

había un abandono de esta infraestructura de eso

por lo tanto tiene una importancia estratégica política muy grande el que hoy hayamos sido capaces de revalidar con toda las cautelas habidas

simplemente quiero mencionar para tratar de amortizar algunos de los impactos que puedan tener esas cautelas lo siguiente

su apoyo ha comenzado trasladándonos la historia de ess bilbao efectivamente ess bilbao nace

es algo que no es otra cosa más que eso pero nada más que eso y no poco empieza en dos mil seis con una administración general del estado presidida por el presidente del gobierno

y con una administración vasca presidida por el lehendakari juan josé ibarretxe

a nivel europeo que se salda finalmente con una

en dos mil nueve justamente en junio de dos mil nueve es decir un mes después de que haya el cambio de gobierno ibarretxe al gobierno lópez

con un fin con un ganador muy esperado en europa como era suecia puesto que esta mostrando interés desde un principio

habla señor isasi también de una construcción cuasi inmediata de una instalación que tiene prevista una inversión de aproximadamente mil ochocientos cincuenta millónes de euros

está bastante en el aire a pesar de que están en un

recogida constante y permanente de incorporaciones en este momento

alemania y francia han presentado su propósito de entrar pero claro con una cuantía dineraria

de los mil ochocientos cincuenta millónes de euros que estamos hablando por lo menos para la gran instalación

inalcanzable para lo que por lo tanto garantizada hoy su incorporación está la de

la de dinamarca y alemania y francia empiezan a presentar alguna propuesta le puedo decir que su preocupación señor isasi de los terrenos en la construcción es una cuestión de voluntad política la voluntad política de los órganos de gobierno de ess bilbao puede perfectamente arreglar este panorama porque la licitación prevista para la ingeniería que habrá que construir el edificio sede está preparada ya

es decir cuando ya abandonó la presidencia de consejo rector esto es en junio del dos mil doce porque por rotación entra

es cuando tenemos la mala noticia del consejo de la abogacía del estado afirmando que tiene que haber una entrega de terrenos

sé de su interés durante todo el tiempo por esta gran infraestructura se ha interesado más allá incluso de los tramites parlamentarios efectivamente tuvimos

que todo este parlamento conociera bien lo que era la infraestructura precisamente a instancias

parlamentario de aralar y al señor etxebarria también le agradezco mucho su apoyo y también al resto de miembros de la cámara a upyd y quiero decirles señorías que no nos podemos dejar pasar esta oportunidad y que los dos grandes problemas que tenemos en este momento es uno

y que diriman con claridad el próximo futuro esto es muy importante

el proyecto lo merece y se hará así y la siguiente cuestión efectivamente es un desbloqueo de la interpretación que hace la abogacía del estado con respecto a los terrenos de la universidad que han de pasar a ess bilbao para que pueda ser construido el edificio y nada más y muchas gracias y desde luego entiendo que prepararemos

le debe ocupar este tema preparará la visita a ess bilbao y podremos todos ya con más datos y más información preparar